a todas y a todos buenos días señor lehendakari más allá de que los diferentes candidatos propuestos por los diferentes grupos sean

tenemos que decir que upyd no comparte que sea el parlamento vasco quien proponga una terna al consejo general del poder judicial para que este órgano

entre los candidatos propuestos quién ocupa la vacante en una de las instancias más importantes de la justicia vasca como es la sala de lo civil y penal del tribunal superior

estamos en contra de que los partidos políticos sean los que planteen esta terna y por lo tanto que pretendan influir o que influyan finalmente en el nombramiento final que ocupe la vacante en la sala de lo civil y penal del tribunal superior

que la sala donde se produce la vacante es la encargada de investigar y juzgar a los gobernantes autonómicos y parlamentarios vascos que sean acusados

que seamos nosotros que sean los partidos políticos

los que propongamos la terna al consejo general del poder judicial

es una intromisión inaceptable de los partidos políticos en la justicia por lo tanto y por estos motivos upyd no participará en la votación

gracias presidenta con la moción que traemos hoy a debate pretendemos que este parlamento conozca primero y pueda debatir después el plan real

y simplificación del sector público de euskadi hablo de un plan real o supuesto porque el gobierno del señor urkullu no se ha distinguido hasta la fecha precisamente

lo desmiente al día siguiente de hecho casi se ha convertido en un clásico en este gobierno el espectáculo de contradicciones internas en las que el lehendakari un día sí

quizás es porque el señor erkoreka no ha estado muy fino últimamente y podríamos tener cierta comprensión con esas contradicciones en un gobierno que rebosara actividad

que no parece el caso precisamente de este gobierno un gobierno que hasta la fecha se ha tomado la supuesta emergencia nacional en la que vivimos con una pasmosa tranquilidad aunque la última semana parece que le ha dado un cierto espasmo de actividad

el pasado ocho de enero que el lehendakari había presentado en el consejo de gobierno un plan para reducir el entramado público de euskadi un plan con objetivos muy concretos

con el compromiso eso sí de que el empleo público no se resintiese con esta reducción pero lo que

para el lehendakari no pasaba de ser un conjunto de reflexiones generales sobre la reducción del sector público

ni desde luego un calendario concreto para ponerlo en marcha esto al menos es lo que el lehendakari nos comunicó en respuesta a preguntas que le planteamos desde este grupo no es ningún invento del partido socialista en respuesta a la pregunta que nuestro grupo le planteó

cito textualmente no se trata ni de una propuesta ni de un plan en firme

nos dijo también que no hay valoración económica precisa de lo que se había planteado y que no se han marcado plazos para abordar este proceso no hay fases concretas y predeterminadas decía

de los próximos meses tampoco nos aportó el señor urkullu mayores concreciones en la interpelación posterior

fuera de una declaración de buenas intenciones y principios generales eso sí pero seguimos sin saber los contenidos de un plan que se vendió como tal a bombo y platillo pero que en realidad no ha demostrado ser otra cosa hasta la fecha que una venta de humo

una tomadura de pelo si no se concreta en los plazos que ya se plantearon en este parlamento en fin casi dos meses y medio después de aquel anuncio seguimos sin saber a día de hoy cómo quiere este gobierno ir desarrollando esa reestructuración del sector público con qué calendario se propone trabajar para cuándo quiere tener ese proceso terminado

aunque sea de forma aproximada de cuántas sociedades públicas se quiere prescindir y qué va a suponer esa reestructuración en materia de empleo público seguimos sin conocer nada de ese plan sin conocer nada sobre cómo quiere este gobierno concretar lo que fue

un compromiso electoral primero y un compromiso reafirmado posteriormente por el entonces candidato en el debate de investidura

que es la institución más representativa de todos los vascos tiene derecho a conocer a debatir y a decidir sobre una cuestión que es de gran trascendencia para este país

el primer parlamentario de esta cámara tiene que dar cuenta de sus actos aquí

a los que el actual lehendakari parece que se está empezando a acostumbrar siguiendo el ejemplo de juan josé ibarretxe para eludir hablar

por ejemplo de un programa de gobierno del que los representantes de la sociedad vasca no tenemos ni la menor idea pero que se va a comunicar como se ha anunciado en otros ámbitos externos por supuesto a este parlamento con una total falta de respeto a la institución parlamentaria al parecer lo que el señor lehendakari puede explicar a un conjunto de ciudadanos no ha podido o no ha querido explicárselo antes a este humilde parlamentario

y se publicó en irekia que hasta la fecha por lo que sabemos transmite las noticias oficiales del gobierno vasco y ya pasó lo mismo con el plan de empleo cuyo contenido tampoco se quiso desvelar cuando el grupo socialista le pidió detalles al lehendakari

y el que días más tarde se divulga a los cuatro vientos fuera por supuesto de este parlamento al anunciar ese mini plan que por cierto parece que no ha contentado a nadie y mucho nos tememos con tales precedentes que con el plan del sector público vasco

en este parlamento porque cuestiones como esta que son de gran trascendencia para el futuro de este país siguiendo palabras del propio lehendakari

y en la cuestión que nos ocupa en este debate estamos hablando de cómo tienen que ser las dimensiones de nuestro sector público en el futuro para hacerlo más operativo y útil para los ciudadanos

y del conjunto de nuestra sociedad de cómo evitar duplicidades ineficiencias que despilfarran recursos que necesitamos

para combatir la crisis y para sostener el modelo económico y social en resumen de dar continuidad a debates y trabajos que ya fueron impulsados y no culminados es cierto por el anterior gobierno socialista porque hay que recordar que en esta como en otras materias afortunadamente no se parte de cero fue con el anterior gobierno

sobre las dimensiones del entramado institucional y de las sociedades públicas un debate

que se va a crear próximamente a iniciativa precisamente del grupo socialista y conviene recordar también porque la memoria a veces es frágil que fue con el gobierno de patxi lópez con el que se empezó a desarrollar un trabajo serio y continuado

para reducir un importante número de sociedades muchas de las cuales no tenían ninguna función más que la de perpetuar

al servicio del nacionalismo como es bien sabido por todos ustedes en todo caso hay un trabajo hecho que es importante

y por supuesto haremos todo lo que esté en nuestra mano para continuarlo y para continuarlo donde se debe hacer aquí en este parlamento que no tiene porque ser

en una materia que afecta de forma importante al conjunto de la sociedad vasca

donde primero conozcamos el plan de gobierno sobre el futuro del sector público y después lo sometamos a debate y exploremos las posibilidades de acuerdo para sacarlo adelante y suponemos que esto es también lo que quiere el lehendakari urkullu que en esta misma cámara y respondiendo a nuestra interpelación afirmó que esperaba obtener el respaldo de las fuerzas políticas a sus planes de reducción del sector público

que están representadas en esta cámara es necesario que el plan del gobierno se remita cuanto antes al parlamento en un tiempo

yo me felicito de haber alcanzado una enmienda de transacción con el grupo nacionalista vasco y con upyd que establece un tiempo razonable para la presentación del plan

se pueda discutir por eso en esa propuesta en esa transaccional que hemos firmado antes de que acabe el actual periodo de sesiones

plantea la propuesta ante la ponencia parlamentaria que se creó al efecto para estudiar la reducción simplificación y racionalización del entramado público vasco este plan presentado por el gobierno y planteamos que este plan detalle

con un calendario en el que se explicite las distintas fases de este proceso y también el plazo en el que dicho plan será completado y por supuesto una valoración de su impacto económico

sí muchas gracias presidenta buenos días de nuevo efectivamente el grupo socialistas vascos nos trae

el entramado público en euskadi es un asunto sobre el que hemos debatido largo y tendido durante la pasada legislatura y también

bueno hablamos y discutimos sobre la materia recientemente hace aproximadamente un mes como consecuencia de que upyd trajo este debate otra vez a esta cámara lo cierto es que la moción planteada por el grupo socialistas vascos puede

un avance en relación a lo que ya se acordó hace aproximadamente un mes por la mayoría de los grupos parlamentarios en esta cámara y

finalmente votado por todos los grupos y si no por todos por una inmensa mayoría de grupos lo cierto es que como digo esta moción que plantea el grupo socialistas

un avance respecto a la transaccional que ya se aprobó hace

como es la tramitación de este plan conforme al artículo ciento noventa y seis y siguientes del reglamento para que se especificara cómo se quiere ir desarrollando la reestructuración del servicio público

que supondría este plan que debería presentar cuanto antes el gobierno

sí que cabe decir que el grupo socialistas vascos

insta pretende instar al gobierno actual al gobierno del partido nacionalista vasco algo que el gobierno socialista no hizo y que upyd le exigió por activa y por pasiva esta es la realidad de los hechos

todos los aquí presentes sabemos qué es lo que hizo el gobierno lópez en esta materia

ahora el grupo socialistas vascos exige al gobierno vasco actual que haga lo que el no hizo y lo que upyd le exigió esta es la realidad de los hechos

estamos dispuestos a apoyar todo lo que supongan avances para la necesaria racionalización del sector público vasco que es uno de los grandes problemas que tiene euskadi

nosotros ya el día cuatro de diciembre del año dos mil doce presentamos una proposición no de ley que tenía básicamente dos objetivos por un lado pedir al gobierno la elaboración de un plan para que fuera presentado en el parlamento vasco y por otro lado digamos que otra de las características de esta proposición no de ley de upyd era la ausencia de un porcentaje específico en esta propuesta porque entendíamos que lo

es que se fueran dando pasos para conseguir que el sector público vasco tenga el volumen óptimo y necesario para prestar el mejor servicio a los ciudadanos a partir de ahí el pasado día siete de febrero es decir hace

se llegó a una transaccional firmada por nacionalistas vascos socialistas vascos populares vascos y upyd una transaccional que

un avance respecto a todas las transaccionales que se firmaron la legislatura

una enmienda de transacción que creo que recogía perfectamente bien qué era lo que había que hacer y cuáles eran los pasos que debían darse para redimensionar el sector público vasco como digo el grupo socialistas vascos

pretende ir más allá pretende ir más allá y creo que es un buen paso y por eso nuestra enmienda de totalidad de tres puntos lo que viene a recoger

los dos puntos que ya se aprobaron en este parlamento hace mes y medio pero donde incluíamos también la reivindicación o la propuesta concreta del grupo socialistas para que este plan fuera debatido en comisión y por lo tanto pudiera también recoger las aportaciones de todos los grupos lo cierto es que

mucho sobre la materia en los últimos tiempos lo cierto es que se ha demostrado sobradamente que muchas de estas entidades empresas públicas semipúblicas

otro objetivo en el momento de su creación que servir a los intereses de los partidos políticos que las impulsaron en lugar de ser un instrumento eficaz y eficiente al servicio del conjunto de los ciudadanos vascos en ocasiones se crearon para soslayar los controles más estrictos

y en numerosas ocasiones para actuar sobre materias en las que no se tenía competencia muchas de estas empresas no han servido ni sirven a los intereses generales de los ciudadanos vascos no han incentivado ni incentivan la actividad económica no han ahorrado ni ahorran costes no han aportado ni aportan valor añadido a los poderes públicos vascos no sirven para que los ciudadanos reciban un mejor servicio al contrario se han convertido en gastos superfluos

y en nido de amiguismo nepotismo y opacidad esta es la realidad de los hechos y la realidad que debe modificarse de manera urgente el objetivo

más moderna más eficaz más eficiente y menos costosa reitero lo que ya dije en el debate del día siete de febrero

idea de redimensionar el sector público no ataca lo público en absoluto lo que hace es atacar lo opaco atacar el amiguismo lo superfluo lo innecesario y lo ineficiente y esperamos

transaccional que hoy vuelve a firmarse y que volverá sea un nuevo paso para avanzar en esta dirección efectivamente de la enmienda de transacción el primer punto y el tercer punto ya se aprobó

se incluye finalmente que este plan sea presentado ante el parlamento vasco para que pueda ser discutido en el seno de la ponencia parlamentaria que estudie la revisión del entramado institucional vasco esperamos que este segundo punto en concreto

que se pospongan las medidas necesarias para reducir el entramado público eso es lo que esperamos que efectivamente

a la comisión o a la ponencia mejor dicho que no implique que se pospongan otra vez las medidas absolutamente indispensables y necesarias para

esto supusiera que los plazos se

pues lógicamente upyd volverá a traer este asunto a este parlamento en todo caso como digo hemos firmado esa enmienda de transacción

que sea y sirva para que el gobierno vasco haga lo que

el sector público vasco que actualmente es una rémora evidente para salir de la situación de crisis en la que nos encontramos y para que se pueda prestar un mejor servicio

menos mal señor pastor que habíamos llegado a un acuerdo de todas maneras después de escucharle a usted me voy a reafirmar en lo que

que dar trigo el partido socialista cuando tuvo la ocasión de dar trigo no lo hizo y ahora se está dedicando a predicar y yo quiero contraponer ese modelo con el modelo del pnv y con el modelo que está siguiendo el modelo del señor y es que yo quiero poner en valor que el gobierno del señor urkullu está predicando con el ejemplo

y cumple con los compromisos adquiridos y esta semana lo hemos podido comprobar el lunes tal y como ha hecho usted referencia se presentó el plan de empleo centrado

el martes se aprobó el programa de financiación para las pequeñas y medianas empresas se ha producido ya

y en un tiempo record se han presentado los presupuestos el anteproyecto de presupuestos de nuestra comunidad mamiari

dugulako orduko akordioa baliagarria delako oraindik ere y la moción presentada inicialmente por el partido socialista

un plan de reordenación y simplificación para su tramitación conforme al artículo ciento noventa y seis del reglamento esto es un pleno monográfico con propuestas de resolución si esto prosperaba el parlamento vasco iba a dictar al gobierno las condiciones del plan el compromiso del gobierno es conocido

aprobada el gobierno presentará la estrategia o el plan de redimensionamiento en el que se contemplará la metodología para afrontar dicho plan los plazos y el análisis por supuesto que el parlamento tiene derecho a conocer sobre este plan pero su aprobación corresponde en todo caso al gobierno que lo hará en base a los análisis y a los informes que realice para cada uno de los ámbitos en definitiva esta es una cuestión que forma parte de la capacidad de autoorganización

se ha suprimido la referencia al artículo ciento noventa y seis del reglamento y el plan se presentará en la comisión creada para la revisión de nuestra arquitectura

y la moción consecuencia de la misma en el supuesto de que estuviéramos en junio y si estando en junio el gobierno no hubiera hecho sus deberes y no hubiera presentado el plan

hoy es veintiuno de marzo ha transcurrido un mes y medio y el gobierno dispone aún de plazo para cumplir con lo mandado por esta cámara pues bien a pesar de este espacio tan breve de tiempo

y el redimensionamiento de nuestra administración y así lo manifestó el señor lehendakari

de la interpelación y efectivamente ya son tres los pasos que se han dado por parte del gobierno uno se ha clarificado el mapa se ha situado a cada entidad

dos se ha aprobado una propuesta de trabajo cada departamento y cada consejero dispone de una propuesta de trabajo para el redimensionamiento del sector público y tres el gobierno ha comprometido diferentes objetivos para la presente legislatura

el gobierno se ha comprometido en reducir en al menos el veinticinco por ciento del total de sociedades públicas entes y organismos autónomos respetando eso sí siempre los siguientes principios la concertación el mantenimiento de los servicios esenciales y el mantenimiento del empleo público el objetivo es

la eficacia sin perjudicar los servicios que prestan estas entidades se trata de evitar actuaciones dispersas se trata de aumentar las sinergias y se trata

entiendo que el gobierno socialista hizo esfuerzos en este sentido pero la verdad es que no obtuvo los resultados esperados y confío en que ahora sí que ahora el nuevo gobierno cumpliendo con su palabra conseguirá los objetivos que se ha propuesto y tal y como decía en su interpelación señor pastor al final acabará felicitando al señor

ya nos lo ha recordado un portavoz que está permanentemente atento a estas cuestiones que los avances del gobierno socialista

muy insatisfactorios y por no decir prácticamente nulos y usted señor pastor nos ha vuelto a poner como ejemplos las medidas que ustedes tomaron en

en su día nosotros hicimos un riguroso seguimiento de las medidas adoptadas en industria y le tengo que decir

reducido los altos cargos pero eso no es cierto lo único que hicieron es suprimir la coletilla de altos cargos

y mantuvieron el número de personas con las mismas retribuciones con los mismos y lo único que pasaron a tener una relación laboral ordinaria con los agravantes que ellos supone por lo tanto no nos ponga de ejemplo el departamento de industria porque no nos vale también se ha referido a redes clientelares

el ejemplo de lanbide porque le voy a recordar que en reiteradas ocasiones el gobierno socialista

cámara en el sentido de que le instábamos una y otra a vez a que cumpliera con los principios de igualdad mérito y capacidad

lanbide en definitiva para que uno resulte creíble sus declaraciones sus propósitos

en esa dirección y ustedes pueden comprobar que efectivamente el gobierno ha cumplido con la palabra dada

en un veinte por ciento tanto los altos cargos como el personal eventual y esto es muy sencillito de comprobar basta con ir al proyecto de presupuesto dos mil trece y la cifra de la reducción del veinte por ciento en altos cargos y en personal eventual y hablaba el señor pastor también de contradicciones pues mire para contracciones señor pastor pues las de su grupo no por cierto que uno de los primeros compromisos públicos del lehendakari patxi lópez

y de los asesores en al menos un diez por ciento y le tengo que recordar que no lo cumplieron

presupuesto dos mil nueve dos mil diez y era una reducción del tres por ciento comparativa presupuesto dos mil nueve dos mil diez y mire el señor

con un objetivo mucho más ambicioso el doble y cumpliendo con la palabra dada ya de saque desde el inicio zentzu honetan gobernua

gracias señora presidenta muy buenos días desde el grupo

la reforma y racionalización de la administración pública vasca en aras a aumentar su eficacia

en concreto y repasando los antecedentes de este tema en las diferentes legislaturas podemos encontrar manifestaciones en este mismo sentido allá por los años noventa del entonces vicelehendakari ibarretxe que evidentemente olvidó

ya que no solo no abordó esa necesaria racionalización sino que lo agravó

ha suscitado a través de diferentes iniciativas este debate

una prioridad para los diferentes ejecutivos nacionalistas

de que la necesaria reforma de la administración fuera uno de los puntos en los que se basara

el contexto económico también creemos que ayudó y que puede ayudar en este momento dadas las necesidades y la presión de la propia sociedad cuando hablamos de reforma de la administración nos referimos a su excesivo peso

de las duplicidades y de la opacidad de la red de sociedades fundaciones y organismos para ello es necesario romper con la rutina con la inercia de más de treinta años pero sobre todo y esto es lo más difícil

en esta materia el gobierno anterior trabajó en la llamada estrategia euskadi dos mil trece y tal y como ya advertimos entonces señor pastor a ustedes siempre se les ha dado mejor eso de poner nombres pomposos que las medidas de ajuste

de su mandato ha variado en algo eso es de justicia reconocerlo pero no podemos decir que haya sido un gran cambio respecto a lo que heredaron y quisiera recordad en este momento la portavoz del partido nacionalista vasco se ha olvidado de algunas medidas que se tomaron y que el partido nacionalista vasco votó en contra como por ejemplo la defensoría de la mujer o

que venían a solapar algunas funciones que ya tenían otras instituciones y que realmente se demostró que no servían para nada

y habida cuenta y por las distintas y reiteradas manifestaciones de miembros del gobierno y en concreto del lehendakari urkullu con motivo de la interpelación que da origen a esta moción parece que comparten

sin embargo los discursos deben de ir acompañados de una real voluntad política y de un listado de intenciones consideramos que se debe concretar avanzar

nos parecía acertada la moción presentada por el señor pastor en sus justos términos y también vemos

a la que se ha llegado recoge el espíritu de esa moción creemos que es concreta que es exigente

nuestro grupo apoyará esta enmienda de transacción porque creemos que insta al gobierno a presentar esa hoja de ruta concreta con plazos y que permita un seguimiento por parte de este parlamento para finalizar quisiera plantear dos cuestiones

quizás nos ocurre en este parlamento muchas veces que hablamos de la racionalización de la administración pública de adelgazar esa administración pública

cuando planteamos este tipo de cuestiones porque cuando hablamos de racionalización cuando hablamos de adelgazar la administración

presenten medidas concretas luego hay que tener coherencia y ser coherente porque racionalizar qué significa quizás nos deberíamos poner primero de acuerdo a qué llamamos racionalizar la administración

la representante del grupo nacionalista vasco cuando nos ha hablado de coherencia en este sentido ha hablado

ha reducido en un veinte por ciento los altos cargos reducción de personal pero es que tampoco se entendería que este gobierno hubiera venido

con un veinte por ciento más de altos cargos para luego decirnos que tenemos un presupuesto

no creo que se pueda presentar ante la sociedad vasca con ese discurso pero yo creo que sí hay que ser valiente y venir a esta tribuna y

funcionarios de un departamento a otro pero mantener absolutamente el gasto en los mismos términos de qué estamos hablando cuando hablamos de racionalización

eso es lo que está planteando el partido popular pero en cuanto el gobierno ha aprobado el primero decreto

el resto de grupos se ha echado encima por tanto yo creo que este debate hay que hacerlo con seriedad hay que hacerlo con coherencia y sabiendo que cuando a un gobierno se le está pidiendo la racionalización de la administración tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos pidiendo

puede tener unas consecuencias en cuanto a la plantilla de esa propia administración

en qué consiste porque aquí hablamos de racionalización de la administración pero nadie dice en qué consiste esa racionalización

sería importante que también nos manifestáramos en ese sentido porque hacerla más eficaz

adecuarla a la necesidades de la sociedad todo eso

pero cómo se hace eso en qué consiste yo creo que precisamente las dificultades que han tenido los diferentes gobiernos para poner en marcha un plan de verdad de racionalización de la administración va en este sentido yo creo que sería importante que el resto de grupos parlamentarios vinieran aquí y dijera en qué consiste esta racionalización de la administración

tenemos ocasión de conocer cuál es la verdadera intención de este gobierno en este sentido

de un análisis de unos presupuestos que nos ha presentado estamos en el trámite

de esos presupuestos y ahí podemos ver claramente

y salvo que la representante del partido nacionalista vasco me indique lo contrario poco encontramos de esa racionalización en estos presupuestos

sobre todo en inversiones pero poco encontramos

la manera de evidenciarla y de plasmarla es en unos presupuestos por tanto

para hacer realidad lo que todos aquí tenemos muy claro no de esta legislatura

señor maneiro de los años noventa en que ya se hablaba de este tema

ningún ejecutivo ha sido capaz de llevarlo a cabo muchísimas gracias

la misma cuestión el debate es idéntico a aquel que tuvimos

y un cronograma en la fase de este proceso de reducción o adelgazamiento de la administración

elaborar aquel plan lo lógico sería que en aquel mismo plan se incluyera estos puntos tanto el impacto económico como un cronograma

muy similares a las que se presentaron a aquella proposición no de ley consideramos que ya se ha defendido o se ha debatido suficiente en esta cámara sobre este aspecto

pero aún no tenían un plan cerrado de todas maneras volveremos a debatir sobre esta cuestión cuando el gobierno nos presente su plan

en eh bildu no estamos en contra de que se realice una reflexión sobre los servicios que se ofrecen desde la administración así como de los que se ofrece desde el sector privado

y aquí el problema ya lo dijo mi compañero en el anterior debate

las conclusiones que el propio estudio la reducción del veinticinco por ciento del total de las sociedades públicas de entes y de organismos participados esa conclusión ya está sobre la mesa efectivamente hace falta una reflexión sobre el entramado público y tal vez una reorganización del mismo pero discrepamos de esa tentación que tienen ustedes

resulta que la conclusión podría ser otra podría ser que en lugar de tener que reducir el entramado público igual hay que ampliarlo y ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía

que los ofrecen como buenamente pueden ofrecerlos gracias a la solidaridad de muchas personas voluntarias que trabajan en los mismos

agonizando por la inquietud de si recibirán o no la pertinente subvención

y qué decir de los servicios que se ofrecen desde las empresas públicas del estado se ha reflexionado sobre la conveniencia de ofrecer solo esos servicios desde la administración pública vasca

de racionalizar los recursos seguro que sí azaldutako guztiagatik

parece que hay y me congratulo de ello un alto grado de acuerdo en este tema pero no dejaré de hacer algún comentario

y daría la impresión de que se trata de racionalizar una especie de entramado público con una constelación de sociedades

con el gobierno socialista anterior y si hay algún partido político responsable de la creación de esa galaxia de entidades sociedades

es evidente que han sido los gobiernos nacionalistas que han gobernado ininterrumpidamente en este país hasta la llegada del gobierno socialista con alguna colaboración puntual en alguna ocasión del partido socialista pero evidentemente la responsabilidad fundamental

de su enorme preocupación por simplificar la administración pública vasca

en todo este periodo en la creación de esta red clientelar sí señora otadui en muchas ocasiones porque en muchas ocasiones al frente de esas empresas y sus sociedades

sino militantes del pnv de reconocida trayectoria que es otra cosa muy distinta

que por qué le traemos esto aquí que total ya vendrá en junio no se preocupe que en junio si no viene volveremos a pedir evidentemente la presentación del plan

de dos propuestas no en este parlamento por supuesto sino ante la opinión pública que las han vendido como si fuera una novedad mundial y no dejan de ser más que la continuidad de aquellos programas de avales de empleo que ya tenía en marcha el otro gobierno que ustedes se niegan a reconocer

de unas cuantas cosas y por supuesto fuera de este parlamento como parece que quieren hacer ustedes hoy mismo también para presentar el programa de gobierno

es que lo estoy leyendo en irekia y en el periódico del régimen también lo leí que se hacía hoy

en un encuentro para celebrar los cien días pero son esas formas de funcionamiento las que a nosotros nos obligan a exigir que sea aquí en este parlamento donde se traigan estas cosas y por supuesto no le quepa a usted duda de que si este plan se trae

en felicitar al lehendakari por haber cumplido los objetivos

tranquilizar que no es desde luego ni voluntad ni intención del partido socialista cuando hablamos de la racionalización de la administración de privatizar servicios públicos ni de privatizar empresas para que se dejen de prestar por los servicios públicos se trata de eliminar todo aquello que es ineficiente sobrante que no se sabe muy bien si se dedica a algo siquiera pero no tenemos nosotros la privatización en la cabeza no sé si los señores del pp hablan de una cosa o de otra yo puedo hablar

ni la vocación de esta propuesta ni el fin último que pretendemos que se consiga

y es verdad que pueda ser poco lo que se hizo pero es la primera vez en la historia democrática de euskadi en la que se puso en marcha un plan que no acabó como tenía que haber acabado probablemente y todos probablemente hubiéramos podido pedir más pero habrá que reconocer al menos que el anterior gobierno señor maneiro fue el primero

vamos a ver algunas verdades que creo que son objetivas el gobierno de lópez no hizo lo que tenía que hacer en este asunto es una obviedad el grupo socialistas vascos exige ahora

creo que es otra verdad objetiva todas las iniciativas de upyd durante la pasada legislatura en este sentido

la racionalización del sector público todas las iniciativas de upyd fueron laminadas

la mayoría parlamentaria constituida por el partido socialista de euskadi y el partido popular y desde luego también por el resto de grupos pero esto es una verdad objetiva podemos echar la vista atrás y comprobar que efectivamente fue así todas las iniciativas de upyd en este sentido fueron contestadas con enmiendas a la totalidad del grupo popular y del grupo socialista que después pactaban entre ellos una enmienda de transacción para venir a decir algo así como señor maneiro no se preocupe

pero poco a poco creo que esta es una verdad objetiva efectivamente es otra verdad objetiva que el pnv creó esa

pero insisto el gobierno lópez no hizo prácticamente nada para acabar con esa red clientelar no hizo nada

estamos debatiendo sobre la materia insisto espero que el hecho de que este

y en la aplicación de esas medidas que son urgentes y necesarias insisto

y que años después se volvía a hablar de estas cuestiones posiblemente

pero no se trata de hablar de este asunto sino que se trata de aplicar las medidas necesarias para racionalizar el sector público

esta es la realidad por lo tanto de lo que se trata no es de hablar sino de exigírselo al gobierno de turno cada uno con sus fuerzas ese es el

nosotros la pasada legislatura teníamos un parlamentario esta legislatura tenemos un parlamentario también pero es que la pasada legislatura ustedes y ustedes tenían mayoría parlamentaria para poder haber hecho lo que ustedes dijeron que iban hacer y no hicieron esa es la realidad por lo tanto señora quiroga no se trata de hablar de este asunto que llevamos años y llevan ustedes años

al gobierno y también desde la oposición sobre todo cuando se tiene una posición fundamental o que puede ser fundamental utilizar los votos y la fuerza de cada uno obligar al gobierno a que tome estas medidas para nosotros la racionalización de la administración no es despedir funcionarios señora quiroga

para nosotros racionalizar la administración es cerrar todos los entes opacos e innecesarios que son muchos reducir estructuras reducir altos cargos y reducir jefes que han sido puestos a dedo

la racionalización no despedir funcionarios señora quiroga nosotros lo tenemos claro tenemos absolutamente claro que de esto se ha debatido mucho en este parlamento

que no se han tomado las medidas necesarias ni por anteriores gobiernos ni por el gobierno anterior

para racionalizar el entramado empresarial que existe

insisto es un verdadero lastre para salir de la crisis y para modernizarnos internamente que buena falta nos hace espero que esta transaccional

lo que hay que hacer en todo caso no son palabras lo que necesitamos sino sobre todo hechos ni siquiera son tanto enmiendas de transacción

medidas concretas para que todo esto que parece ser una mayoría de grupos consideramos indispensable pueda de una vez

reflexión en torno a esta cuestión que la dejó el señor ibarretxe la octavo legislatura se le vuelve a olvidar y le quiero recordar que esto

ya lo hicimos en la legislatura anterior en la diputación foral de bizkaia por lo tanto

al señor pastor se le vuelve a olvidar sus responsabilidades en los gobiernos de coalición no sé si

gobiernos de coalición y nos vuelve a hablar del clientelismo yo le quiero

señor pastor que los únicos condenados en relación a estas cuestiones aquí en nuestra comunidad lo fueron por el caso

se lo quiero recordar claro que el programa de avales de financiación para las pequeñas y medianas empresas no lo ha inventado el gobierno del lehendakari urkullu si es que eso ya lo sabemos ya en el dos mil ocho el lehendakari

empezaron a detectar que las pequeñas y medianas empresas tenían problemas para acceder a la financiación

con quinientos millónes de euros quinientos millónes de euros que la ejecución fueron de quinientos veintisiete y que fue

aguirre programa que había recibido en herencia del gobierno del señor ibarretxe

tradición entre nosotros tradición que ustedes no quisieron seguir

en su presupuesto obviaron este programa no lo presentaron y nuestro grupo a través de una enmienda intentó que el programa

ustedes unieron sus votos con los del partido popular

nos quedamos sin este fondo de financiación en los presupuestos del dos mil doce cuando años antes el señor consejero lo había calificado de exitoso a la señora quiroga decirle que la concreción que está pidiendo usted en estos momentos lo traerá el gobierno cuando el plan y decirle que los efectos de este plan tendrán reflejo en los sucesivos presupuestos pero reiterar repetirme

en este primer presupuesto del dos mil trece ya se recoge la reducción del veinte por ciento de los altos cargos y del personal eventual

recordarle que sí que es cierto que ya se están viendo las primeras medidas y que se ven en los presupuestos eta bilduko ordezkariari

sinceramente después de escuchar a los diferentes grupos

se vaya a llevar a cabo esa reducción ese redimensionamiento de la administración porque

creo que es hacer un ejercicio de engaño señor maneiro el decir que queremos suprimir empresas públicas y decir

a los ciudadanos o es demostrar una ignorancia total porque solo hay que ver cuál es el organigrama de las sociedades públicas para darse cuenta que

a dedo pero el resto son administrativos son empleados públicos

es que esta es la verdadera cuestión que eso es lo que no quieren abordar usted se cree que

no somos conscientes de que hay empresas públicas que serían perfectamente suprimibles y que la administración otra

esas competencias ese servicio público claro que sí cuál ha sido el problema que se ha creado una

que ahora es difícil porque lo que estamos hablando es de personas

y por eso es muy fácil que el gobierno diga que viene aquí con un veinte por ciento menos de altos cargos

un nuevo gobierno con lo cual no tiene que cesar a nadie si dentro de un año le pedimos que reduzca un veinte por ciento respecto a lo que ha nombrado ahora

yo creo que hay temas a los que ya tenemos que hablar claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas y por eso no se ha producido durante todos estos años

cuando vea con hechos en un presupuesto dónde se reduce en este presupuesto no lo hemos visto no hemos visto que se reduzca ninguna sociedad pública ninguna fundación hasta lo que nosotros hemos podido ver del presupuesto

los altos cargos sí pero por lo que le decía porque es que no pueden venir con un

que el ejecutivo anterior con menos presupuesto por tanto yo creo que

podemos seguir mareando la perdiz mareando la perdiz mareando la perdiz pero que ya ha llegado el momento y yo creo que el momento de crisis económica que estamos viviendo es

estos temas pero también desde la coherencia y si al gobierno le vamos a exigir que nos traiga ese plan de racionalización luego tendremos que ser coherentes también el resto de grupos cuando se planteen algunas medidas que puedan ser difíciles y complicadas porque este es el momento en el que estamos

dentro de seis meses con esto mismo hablando todos de la necesidad de la racionalización de la necesidad de suprimir sociedades públicas fundaciones y demás

se consiguieron reducir algunas cosas y he hablado de la defensoría de la mujer y he hablado de la defensoría del menor que eran casos

pero fuera de eso y salvo algunas sociedades públicas que ya se han dicho aquí de la consejería de agricultura que también eran muy cantosas y ya aquello no había quien lo pudiera mantener

mi partido está tomando decisiones en el gobierno de españa muy complicadas porque van en esa dirección porque eso es gobernar tomar esas decisiones y algunas son muy complicadas

está a la altura de las circunstancias o sigue mareando la perdiz también con este tema y por hablar también como se ha hablado del fondo famoso

tenemos un fondo suficiente para poder afrontar una situación complicada muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea eta amaitzeko

defendiendo el discurso viciado a favor de la reducción del entramado público no queremos poner el foco en las propias estructuras o sociedades sino

qué servicios públicos dignos y de calidad debe garantizar sí o sí la administración pública esa es la cuestión porque nos parece peligroso el discurso

públicos que se están ofreciendo desde estos entes públicos compartimos la reflexión de suprimir lo superfluo e innecesario pero tendremos que definir también

e innecesario para nosotras todo aquello que no cuestione el sistema público de calidad

y esa revisión en cualquier caso traiga mejoras respecto a la situación actual

decir que no sobra empleo público que incluso estamos por debajo de la media europea eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea eztabaida amaituta

quiero empezar diciendo que no es que esta parlamentaria sea monotemática

pueden creerme ni que tenga una especial fijación con la justicia gratuita si traemos de nuevo aquí esta cuestión de corregir las disfuncionalidades del decreto ciento diez barra dos mil doce regulador como decía de la justicia gratuita

y no acaba de dar solución a los problemas generados por la nueva regulación dando cumplimiento además a lo aprobado en esta cámara y si siempre es de recibo a nuestro juicio el cumplimiento de las resoluciones de esta cámara

de ese cumplimiento deriva el garantizar el ejercicio de un derecho como es este caso

de garantizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva ejercicio seriamente afectado por este discutido decreto como tantas veces hemos dicho en esta cámara

y la regulación introducida por el controvertido decreto es todo menos adecuada

es responsabilidad de este gobierno y este gobierno a día de hoy no ha cumplido todavía con esa responsabilidad esta cámara aprobó el treinta y uno de enero instar al gobierno vasco a corregir las disfunciones del decreto doscientos diez barra dos mil doce el señor erkoreka

también se comprometió a hacerlo pero lo cierto es que aunque ha habido conversaciones no se ha avanzado y que los problemas que yo he relatado aquí en numerosas ocasiones

nosotros trajimos en primera instancia a esta cámara la derogación del decreto pero en aras de llegar a un consenso y a un mandato parlamentario dirigido al ejecutivo finalmente llegamos a una enmienda de transacción con el grupo nacionalistas vascos y lo que se aprobó en esta cámara

para solventar las disfuncionalidades planteadas por el decreto ciento diez barra dos mil doce como dijimos el treinta y uno de enero y en la sustanciación de la interpelación dábamos así un voto de confianza al gobierno con el fin de que se pusiese manos a la obra

y ese mismo voto de confianza fue el que dieron los colegios profesionales

y que las medidas de protesta que tenían previstas las suspendieron

en esa interpelación esa oportunidad no fue aprovechada se traicionó en cierta medida nuestra confianza y la confianza de los profesionales esas conversaciones no llegaron

por ello los letrados finalmente formalizaron la demanda el dieciocho de febrero

de bizkaia fue cerrado y se anunció el cese de la designación de letrados de guardia y el cese de las designaciones de oficio es decir como dije lo que se conoce como una huelga a partir del uno de marzo este grupo presentó la interpelación al consejero de justicia para conocer cómo iba a dar cumplimiento al mandato parlamentario

la recibieran los colegios de abogados un miércoles a la mañana dos días antes de la huelga de los profesionales y dos días antes también de la comparecencia

en ese momento el señor erkoreka esos días nevó mucho en vitoria y probablemente eso fue lo que provocó los retrasos

porque como también le dije no tengo ninguna duda que ni las medidas de presión

nada que ver con la remisión de esa carta y con el avance en las conversaciones

no acabó de concretar en su respuesta cómo iban a solucionar los problemas planteados para garantizar el acceso a la justicia gratuita y cuáles iban a ser el cronograma de reuniones

el calendario señaló que no nos lo podía dar pero que había un plan y un marco para llevar a cabo lo solicitado en la iniciativa y que las cuestiones que yo planteaba estaban siendo objeto de estudio y tratamiento conjunto con los colegios de abogados con el fin de dar esa solución satisfactoria para todos

las habrá acercamientos los habrá pero es que las medidas concretas no acaban de llegar y por esto este grupo pensó que tal vez ese mandato parlamentario era tan genérico que dificultaba su cumplimiento

a su moción y también se refleja en la enmienda a la que al final hemos llegado con el grupo

se introduzcan cuestiones concretas que darán lugar a un correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita para todos los vascos que es lo que pretendieron desde un principio los colegios en la negociación del decreto y lo que movió

cuestiones que fueron planteadas a este nuevo gobierno desde el principio y que como dije van más allá de los casos fallidos por mucho que algunos quieran sumarse a esa posición mantenida por el gobierno anterior

iba mucho más allá yo hice referencia en esa interpelación a una serie de cuestiones que las he traído hoy aquí en esta moción

aprobación para la que ahora solicito a todos su apoyo para que de aquí salga un mandato más concreto que el que salió el treinta y uno de enero

es la necesidad de la simplificación de los trámites trámites muy enrevesados no solo para los beneficiarios de la justicia gratuita sino también para los propios abogados

se haya producido un atasco tanto en el servicio de orientación jurídica como en la comisión de justicia gratuita por lo tanto como digo una de las primeras cuestiones a resolver

medidas que puedan conseguir esa simplificación de los trámites y además como dije no se puede obligar al letrado a estar más pendiente de un expediente administrativo

no se puede obligarle a quitar tiempo y esfuerzo de la dirección del asunto y por lo tanto es necesario aligerar su papel en la tramitación de la justicia gratuita una segunda cuestión que hemos planteado es que debe hacerse frente al coste de la organización de la prestación de servicio de asistencia jurídica gratuita

procedentes de dinero público y fondos de las cuotas de los profesionales de los que están inscritos en el servicio de justicia gratuita y de los que no lo están porque no podemos olvidar que aunque como hemos dicho aquí en muchas ocasiones el servicio está delegado en los colegios profesionales estamos ante un servicio

debe ser sufragado con fondos públicos y el tercer punto

de los casos fallidos que es procurar que quien realiza un trabajo vea

y lo comparto y lo quiero reiterar hoy aquí estamos hablando de fondos públicos y debemos ser responsables en la utilización de esos fondos públicos

una insuficiencia de recursos para litigar puedan verse beneficiados del servicio de justicia gratuita

recupere esos fondos públicos y todo eso lo compartimos como no podía ser de otra manera este grupo pero como decía también consideramos que quien trabaja debe

el señor erkoreka ha mostrado la intención de crear un fondo para hacer frente a esos casos

no se puede hacer de otra forma bien yo ya puse de manifiesto aquí y hoy lo quiero reiterar que hay muchas reticencias por parte

y de los propios profesionales sobre la consistencia de ese fondo y por ello lo que solicitamos en la enmienda de transacción es precisamente que las condiciones de dicho fondo sean acordadas con los colegios profesionales que este asunto sea también fruto de la negociación entre el gobierno y los colegios

están teniendo problemas a la hora de acceder a la información necesaria para dictaminar si el solicitante tiene derecho a la justicia gratuita o no por ello venimos a instar aquí

que se puedan acceder a esos datos que las diputaciones forales consideren a los colegios profesionales como administración pública a efectos de suministrarle la información pertinente para el pronunciamiento sobre la existencia o no de este derecho como digo con esta iniciativa hemos querido concretar más

los problemas derivados de la inadecuada redacción del decreto no han sido resueltos

el voto favorable de la cámara a esta iniciativa y sobre todo esperamos que el gobierno esta vez sí

y finalmente pueda conseguirse una regulación adecuada que permita
un correcto funcionamiento de servicio y garantizar el acceso a la justicia gratuita de todos los vascos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan

gracias señora presidenta buenos días señorías buenos días a todos

pero lo cierto es que debatimos por enésima vez en este caso

sobre la necesidad de solventar las disfunciones del decreto ciento diez barra dos mil doce de diecinueve de junio sobre justicia gratuita que tanta guerra nos da

ha venido a quedar claro yo creo que es una cosa que ya no duda nadie

aunque ahora la señora llanos hable de tutela judicial efectiva y de cumplir fundamentalmente los mandatos de la cámara es un uno está planteado fundamentalmente por el colegio de abogados de bizkaia

interminable de iniciativas que es efectivamente el caso de los denominados casos fallidos como ustedes ya sabrán

a los abogados supuestamente digo que están adscritos al turno de oficio porque el peticionario de la justicia gratuita o bien

el expediente de justicia gratuita o bien no se le concede el beneficio

y pertinaz insistencia con que la señora llanos afirma en su iniciativa original que el decreto ha venido a empeorar las condiciones de los letrados de oficio

y me afirmo y ratifico en todas las manifestaciones que he venido efectuando

del turno de oficio han mejorado sustancialmente y cuando hablo de condiciones retributivas no solamente hablo de la cuantía de los pagos sino también de los plazos de pago

pero hay una diferencia sustancial entre usted y yo señora llanos yo traigo pruebas usted solo retórica

partido judicial de eibar que es el que le puedo

turno de asistencia al detenido en el dos mil once incluida la rebaja del siete por ciento establecida doscientos cuarenta y ocho coma cincuenta y siete un treinta y uno por ciento más

partido judicial de eibar porque claro luego tampoco ocurre que nadie sabe exactamente cómo se pagan las cosas

ni no todos los territorios pagan igual separación o divorcio contencioso de seiscientos cuarenta y uno

no hay comparación con lo que se paga en nuestra comunidad en relación con otras comunidades autónomas que tienen trasferida

servicio ni con lo que paga el ministerio le voy a enseñar

lo que cobra un abogado gallego al trimestre

euros por el turno de oficio al trimestre nosotros como le digo doscientos cuarenta y ocho al día

eso es lo que se llama justicia gratuita a precio de saldo sigamos

a la cuestión principal a cuál es el origen el fin y por qué se establece el decreto de justicia gratuita había que conseguir una serie de logros que no existían antes

se produce un mayor control que es lo que preocupa a los colegios de abogados no a los abogados se consigue transparencia porque se paga lo que se tiene que pagar

lo dice el consejero de justicia en sede parlamentaria y lo dice cualquier persona que tenga sentido común porque existe una ley reguladora de la que ya hemos mucho y que no voy a repetir se han ampliado los

dos decretos para no extenderme hay una libre elección de abogados con limitación de cupo eso que a ustedes tanto problema les supone

igualar a personas que no tienen capacidades económicas para elegir abogado con las que sí lo tienen no sé por qué

comunidad que ustedes gobiernan existe la organización de los turnos de guardia de asistencia al detenido mejora sustancialmente si efectivamente se cumple lo que

en las sedes judiciales de todos los partidos judiciales de la comunidad

no hay discusión entiendo pero por si acaso lo digo y habilita a todos los colegios del quantum para esos gastos de funcionamiento etcétera de los que luego hablaremos a inicio del ejercicio yo creo que esto no tiene discusión ahora vamos a ver lo que usted solicita en su proposición original y vamos a empezar a hablar por el servicio de orientación jurídica el servicio de orientación jurídica digamos efectúa los trámites para

de los expedientes bien usted sabe aunque no lo diga que el gobierno planteó a los colegios la posibilidad de acudir al servicio integral de gestión de la abogacía un sistema informático como un sistema de gestión colegial mayoritario en todo el estado que permite la integración

de las diputaciones por ejemplo del cualquier aplicativo administrativo de justicia gratuita incluso solicitando información económica se rechazó

a día de hoy cada colegio sigue disponiendo de un aplicativo informático diferente

no se ha producido ningún tipo de unión de colegiación de esfuerzos entre los colegios

con el actual decreto la cifra de gastos por gestión ha sido mayor que la abonada anteriormente a día de hoy bizkaia no tiene instaurado un aplicativo informático

su aplicativo informático no está testeado del todo con el aplicativo del gobierno

una serie de déficit estructurales por los cuales dice que no puede

seguimos con el soj con el servicio de orientación jurídica usted propone

para que pueda tramitar los expedientes de una forma digna y eficaz vamos a ser serios no son

de esos gastos de gestión o bien por expediente como se hacía antes por una cuantía por expediente o bien por tramos en función de todos los expedientes que se hayan podido tramitar el año anterior

en dos mil once se abonaron novecientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete coma quince euros con el cálculo que pedían los colegios con el cálculo del gobierno se hubieran pagado un millón ocho mil novecientos cincuenta y dos coma cuarenta y nueve euros

en cualquier caso gastos de gestión de la justicia gratuita más millón de euros añadiendo que los servicios de orientación jurídica están físicamente en los palacios de justicia

hay que decir que todos los asuntos en cualquier jurisdicción necesitan la tramitación y la concesión no se hace ninguna actuación

por el abogado hasta que no se reconoce el servicio por lo tanto

ni se paga salvo en el ámbito penal que mire usted que es amplio

hay que hacer la tramitación ordinaria que son alcoholemias menores querellas y violencia de género parece razonable pensar que estos delitos son de suficiente

para suponer que no todos los autores de estos delitos vayan a tener problemas económicos y por lo tanto ser beneficiarios

en relación con los casos fallidos se propuso por parte del gobierno pagar un importe de dos coma cinco sobre el pib importe total de los turnos de oficio que

que establecían los colegios por el cual se pagaba quinientos ochenta y tres euros por cada caso fallido casi lo que se paga por un divorcio contencioso no creo que esté mal y finalmente solicita la simplificación de los trámites administrativos para que estos no sean un impedimento para el acceso a la justicia liberando a los profesionales

de su realización estos son los decretos que hay que rellenar nombre dni diligencias

cuantía de los ingresos que manifiesta el imputado o el asistido

hombre complejos no parece que sean trabajo no creo que den mucho

pueden fastidiar pero con el tiempo que tenemos esperando a que entremos para

el problema principal usted afirmaba que era innecesaria una reforma del decreto porque se iba a modificar la ley y que además sería su gobierno el que la hiciera francamente señora llanos espero que no espero que no

en la justicia de este país el malestar el desconcierto

en fin en casi todos los operadores jurídicos menos los registradores y notarios que van a tener

un bonito aumento de volumen de negocio el rechazo ha alcanzado

antes le puedo hablar de las tasas judiciales gallastegui andrea amaitzen joan voy terminando

de los jueces sustitutos le puedo hablar de las bodas para los notarios del registro civil privatizado en fin yo creo que lo que tiene que hacer es irse a la calle ver las manifestaciones ver las protestas las huelgas

de sus despachos pequeños que no se presentan demandas reducidas en un treinta por ciento

con una reducción presupuestaria por cierto de más de tres millónes de pesetas en fin

con los abogados es el afán recaudatorio del gobierno del pp es esa consolidación

para la derecha de que la justicia es un servicio pero no un servicio público ni un derecho es un servicio

y los demás que se aguanten y eso es lo que nosotros no

a la enmienda transaccional y como quiera que en su momento ya manifestamos que no íbamos a poner ningún obstáculo a que se solucionaran los problemas fueran las que fueran con una actitud transparente del gobierno

gobernua jadanik neurriak hartu dituela el treinta y uno de enero cuando debatimos sobre el decreto de justicia gratuita expresaba mi deseo de que fuera la última vez que en el pleno debatiéramos sobre las disfunciones

decreto de justicia gratuita y así lo manifestaba porque el departamento liderado por el señor erkoreka se había comprometido públicamente a corregir los problemas detectados en la aplicación del decreto conciliando el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y los legítimos intereses de los profesionales que prestan el servicio

inmediatamente se iniciaron las conversaciones con los colegios de abogados y fruto de estas conversaciones el departamento consiguió paralizar las movilizaciones y entablar el diálogo con los colegios de abogados para identificar los problemas y

el diálogo entre los colegios de abogados y el departamento liderado por el señor erkoreka es fluido de cara a resolver los problemas surgidos

que el gobierno está cumpliendo la palabra dada y está cumpliendo también como no podía ser de otra manera con el mandato de esta cámara en relación a los puntos que se recogen en la enmienda finalmente acordada y en lo que se refiere a la simplificación de los trámites

y de hechos se está estudiando su simplificación sin que ello en ningún caso suponga la desregularización del tema

de tramitar el expediente de justicia gratuita a fin de que solo

aquellos ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los requisitos de lo contrario el sistema sería prácticamente insostenible dicha obligación sin embargo no puede convertirse en un vía crucis para la ciudadanía a la que debemos facilitar en base a los instrumentos disponibles por parte de las instituciones

es por ello que la agilización de los trámites de concesión del beneficio de la justicia gratuita constituye un interés público a proteger toda vez que afecta de plano

se está analizando por el gobierno las diferentes posibilidades que procuren una simplificación tanto a través de contactos iniciados ya con las diputaciones

para que la tramitación sea lo más ágil posible sin merma de la necesaria justificación del servicio y una adecuada utilización de los fondos públicos en relación a que se procuren los medios adecuados para que el soj pueda tramitar los expedientes de una forma digna y eficaz

a que los expedientes se tramiten de una manera más eficaz evitando los posibles colapsos y también se está barajando trasladar la ubicación

a los registros civiles y en cuanto al espacio todos sabemos que eso supondrá una notable mejoría en relación con los fallidos el gobierno vasco ha incluido en anteproyecto de la ley de presupuestos de dos mil trece

para la creación de un fondo que permita sufragar los costes generados a los profesionales letrados por los denominados casos fallidos subvención nominativa a los colegios de abogados extramuros de la justicia gratuita

según nuestra propia normativa de subvenciones y en consecuencia los órganos de control interno de la propia administración

ha de hacerse con una resolución favorable de concesión de justicia gratuita el fondo está dotado de

euros y tal y como ha informado la viceconsejera de justicia se procederá a negociar con las asociaciones profesionales la firma de convenios de colaboración para establecer las condiciones de ese fondo que financiarán entre los colegios de abogados y la administración pública y por último

siendo las diputaciones forales quienes tienen los datos fiscales instamos a las mismas a que los faciliten a los servicios de orientación jurídica y me consta

las gestiones oportunas en este sentido besterik gabe

enmienda de transacción se tomen las medidas adecuadas para solventar las disfunciones provocadas por el decreto procediendo en su caso a la modificación de la normativa

baten justifikatzeko el gobierno vasco se escudaba en el debate reciente que no era preciso realizar un decreto ya que podía entrar en contradicción con la ley de justicia gratuita que

en el congreso español cierto hay un anteproyecto que indica cuáles serán las líneas maestras de esta ley un anteproyecto que

uniformador un anteproyecto que va a intentar centralizar

y controlarlo desde las terminales de madrid ante lo cual pensábamos que era interesante haberse antepuesto haber

y en la capacidad de reglamentar la justicia gratuita que puede tener

dependiendo de las necesidades de este país hacer una arautu

en justicia sabiendo qué necesita el sector se podía haber actuado se debía actuar gobernar es tomar decisiones gobernar es tomar acción gobernar es prever y no vemos al gobierno con energía para hacer defensa de las necesidades de este ámbito no vemos con capacidad de anteponerse no le vemos con iniciativa

la propuesta que hoy se trae vemos que da salida al problema pero una salida que la consideramos parcial lo

porque esperábamos que se dé al sector de los letrados un nuevo marco normativo esperábamos otra cosa baina esan bezala puntu hauek ematen du

gracias de nuevo señora presidenta y buenos días de nuevo a todos y buenos a días al señor erkoreka que antes no le he dicho

en este debate me voy a referir muy brevemente la nueva normativa llegará porque tiene que llegar con arreglo a la nueva ley y se tendrá que adaptar a la nueva ley hay grupos que son discrepantes porque le quieren poner la txapela absolutamente a todo

pero bueno llegará y se deberá adaptar a esa ley que además es un anteproyecto en el que todavía muchos colectivos tendrán mucho que decir y el propio gobierno el propio departamento de justicia consejería de justicia pues también tendrá que decir

simplemente esta parlamentaria antes de presentar la moción

había habido un acuerdo ante sí nos han dicho que ha habido conversaciones y acercamientos pero que medidas concretas

presentado la moción que finalmente hemos transaccionado y que de verdad esperamos que esta vez

queremos todos señora gallastegui

con el tema de la justicia gratuita pero para monotemáticos ustedes nosotros presentamos el tema de la justicia gratuita porque no acababa de haber solución pero ustedes el fraude fiscal lo traen

es el señor maneiro y no porque no se resuelva porque la cosa está más que resuelta pero lo traen una y otra vez o sea que monotemáticos habrá que mirárselo y lo de la retórica también porque yo no sé si de retórica pero la enmienda suya que la voy a leer el parlamento vasco en aras de garantizar el derecho de justicia gratuita a aquellas personas que no tienen medios económicos se muestra partidario

que aúne la necesaria defensa de los servicios públicos y políticas sociales con los principios de eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos y la paz en el mundo señora gallastegui

vamos para retórica esto y luego uno está acostumbrado pero le cuesta cuando las protestas son contra un gobierno del partido popular hay que escuchar las propuestas hay que escucharlas y estar en contacto con ellos y oírlos ahora cuando las protestas son para un gobierno del partido socialista

sordos como tapias y encima justificando la sordera claro y encima justificando

si yo le digo si el decreto hablando en términos coloquiales era la bomba los colegios de abogados por qué protestan por deporte

tienen muchas cosas que hacer muchísimas cosas que hacer como para estar protestando por un decreto que le repito es la bomba

los documentitos que hay que rellenar va mucho más allá de eso y usted lo sabe la tramitación es

farragosos y lo dicen los profesionales que ya le digo es que no lo décimos nosotros lo dicen los profesionales y luego claro

yo de verdad el ministerio de justicia espero que converse mejor que como conversó el departamento de justicia anterior

las conversaciones brillaron por su ausencia brillaron por su ausencia y luego habla usted del tema de la organización de la transparencia y del mayor control cómo si los abogados se negasen a la transparencia y al mayor control

es una falacia han querido hacer ver que los colegios profesionales lo único que quieren es asegurar sus honorarios

y perdone que le diga la justicia gratuita que sea para el que no tiene recursos eso ha sido siempre

y le diré más el gobierno del partido popular lo que ha hecho es garantizar la justicia gratuita para más personas que el gobierno anterior luego también otra cosa que habrá que mirar a ver quién está más a favor de la justicia gratuita y luego el tema de la organización pues claro que se tienen que pagar todos los porque le he dicho es un servicio público y de hecho la consejería anterior de justicia

con crear un servicio propio pero yo creo que cuando vieron lo que le iba a costar un servicio propio

y siguieron delegando ese servicio que es público en los colegios profesionales

de letrados que ni tan siquiera están incorporados al turno de oficio para cubrir todos los gastos están poniendo personal propio y yo creo que la propia consejería reconoce la actual

porque le vuelvo a repetir es un servicio público y se tiene que pagar con fondos públicos que sea gestionado por los colegios profesionales porque le digo son los que mejor lo pueden gestionar porque ya que tienen cada uno una estructura y yo no sé si es que está triplicada la estructura lo

menos mal que se han ido ustedes del gobierno porque si no ya podía ser absolutamente el caos monumental yo ya le digo doy las gracias a quienes van a apoyar esto solicito además como está aquí el señor erkoreka que aproveche

para que de verdad se puedan solucionar estas disfunciones que lo haga de acuerdo con quienes están gestionando el servicio que son los que realmente

día a día y que esas modificaciones de la normativa que se tendrán que llevar a cabo
también se tenga en cuenta la opinión de los mismos nada más y muchas gracias eskerrik asko

buenos días de nuevo señorías la verdad es que voy a empezar por un orden siguiendo las intervenciones

espero que no se me olvide luego nada para contarle algo a la señora llanos bueno señora otadui la verdad es que nosotros estamos a favor de que cualquier disfunción que haya con cualquier normativa la hayamos

a agilizar a dotar de mayor transparencia en fin a mejorar lo que ya no

no ser razonablemente mejorado ahí nos van a encontrar me parece muy bien esto del fondo yo no sé lo que les parecerá a los abogados porque claro ese fondo es una cantidad de dinero que ustedes ponen pero que también tenemos que poner nosotros si no me equivoco porque iba a ser un fondo compartido y la cuantía

son los ciento sesenta mil euros que son exactamente quince mil euros menos

los que planteaba el gobierno anterior al establecer la cuantía en función del porcentaje de fallidos es así

bien la simplificación de los trámites yo cuando digo que los trámites no son complicados hablo de los abogados los anexos son los que son y eso es lo único que rellenan los abogados los

aportar más documentación documentación que obviamente puede ser más fácil traible a los expedientes de justicia gratuita si hay unos convenios con las diputaciones

información al servicio registral para establecer insolvencias por ejemplo

de lo que estamos hablando es de la queja de los abogados para realizar esos trámites que supuestamente no podemos hacer

señora llanos la verdad es que yo lo de la monomanía lo ha vuelto a decir usted porque yo ya le he dicho que le creía es decir que si usted sale a este estrado y dice que no tiene ningún interés específico ni está especialmente obsesionada por el tema de la justicia gratuita yo le creo me dice usted que nuestra enmienda es

y en el ámbito de lo jurídico como usted sabe uno puede tener un discurso estupendo pero lo que vale a efectos de

la actividad probatoria es lo más importante para ganar un juicio como usted bien sabe

que acreditan cuál es lo que viene recogido en el discurso que hemos hecho

de esa enmienda que nosotros presentamos como pájaros y flores no eso es una declaración de principios de principios

qué queremos para los servicios públicos que tenemos que gestionar transparencia qué es lo que no había antes transparencia por qué porque nosotros estábamos estableciendo

dentro del propio sistema de pago de la justicia gratuita el establecimiento de los posibles casos fallidos es decir se paga por caso fallido presuntamente

una cuantía por cada caso fallido la subvención nunca es transparente nunca es transparente porque la subvención se da

es no presentar ningún papel acreditativo de cuáles eran esa cantidad de datos fallidos

y eso es así eso es así y usted lo sabe exactamente igual que yo porque lleva ejerciendo muchos años y por lo tanto sabe exactamente igual que yo cómo llegan las cuentas de resultados para probar en cada junta ordinaria anual

señora llanos por favor no me diga que es farragoso rellenar el nombre y los apellidos y la cuantía que el señor manifiesta que gana en un folleto que esta que son los que le he presentado esos son los anexos que nosotros rellenamos todo lo demás lo hace el servicio de orientación jurídica que como le digo

un millón de euros al año con sede pagada por la administración de justicia de este país un millón de euros de los cuales una parte muy importante como usted bien sabe es gasto estructural de los propios colegios los abogados

para no cobrar algunos de los turnos de oficio como lo han hecho siempre desde que existe la justicia gratuita en este país esto es un problema colegial y colegial fundamentalmente

yo lo único que espero es que terminemos con esto que haya un acuerdo

nos están dando y que no perdamos más el tiempo hablando y repitiendo y reiterando debates

a la ciudadanía que no puede permitírsela si no la paga igual

y en definitiva que además el dinero que los contribuyentes aportamos para el pago de ese servicio

en las cuentas que se presenten anualmente gracias eskerrik asko

en su caso modificación de la normativa berez ez da horren

presidenta señoras y señores parlamentarios

a los socialistas nos gustaría poder compartir con usted y poder compartir con su gobierno una preocupación que fue tratada

y que es también parte de las consideraciones y de las críticas que en estos días estamos haciendo sobre su proyecto de presupuestos que es que el gobierno vasco pudiera contar para los presupuestos del año dos mil trece con el mayor número de ingresos posible

con todos los recursos que en estos momentos están en disposición

de ese presupuesto el objetivo es que este parlamento que es quien está facultado para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma vasca conozca con la mayor y mejor precisión a cuánto asciende la previsión de ingresos por los distintos impuestos que están disponibles o que se pueden disponer de ellos para el año dos mil trece lehendakari

del año dos mil trece no es correcta se lo volvemos a decir hoy la previsión que su gobierno ha hecho a partir del consejo vasco de finanzas hacer los ingresos del año dos mil trece no es correcta y usted lo sabe porque usted lo ha reconocido después se lo volveré a recordar usted sabe que la previsión de ingresos no cuenta con todos los ingresos que se pueden prever y que pueden estar disponibles para confeccionar los gastos del año dos mil trece lo sabe usted lo sabe su gobierno lo sabe la diputación de bizkaia la de gipuzkoa la de álava lo saben todas las instituciones

a la hora de confeccionar el presupuesto porque también las diputaciones forales como todo el mundo sabe participan en la elaboración de los ingresos para que se pueda hacer

sabiendo todo esto ustedes insisten en negarse a computar algunos ingresos y el resultado de esta negativa es

un fraude político para toda la sociedad una sociedad que está esperando saber cuál es la reacción de un gobierno para hacer políticas que le ayuden a enfrentarse a la crisis económica y a los dramas de la crisis económica una sociedad que paga sus impuestos que contribuye a la confección de esos presupuestos como respuesta no tiene por parte del gobierno la devolución de todos los recursos mediante la política de gastos por lo tanto estamos ante un planteamiento que desde el punto de vista político se puede considerar como fraudulento

porque ustedes saben que existiendo esos recursos en estos momentos lo que quieren es aparentar que las cosas están

de lo que ya están que hay que hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios

llegará el día en que ustedes vendrán diciendo que gracias a su gestión se han conseguido más recursos y que hay más recursos avanzado el año para poder hacer otro tipo de políticas eso no es de recibo que en una legislatura

esta en la que el presupuesto arranca a partir del doce de marzo que por lo tanto su aprobación de darse se daría en el mes de mayo

se esté jugando con los recursos para intentar sacarlos después en septiembre en octubre o cuando corresponda y para tratar de

una gestión extraordinaria cuando todo esto está previsto de antemano y se puede hacer de antemano por lo tanto nosotros le vamos a solicitar reiteradamente las veces que haga falta hoy mañana pasado todos los días que el capítulo de ingresos de los presupuestos esté con todos los recursos que son necesarios usted sabe que hay tres impuestos lo comentamos cuando se hizo la interpelación

el de la energía eléctrica y el del juego tres impuestos que sus propios compañeros de partido los propios responsables institucionales que se dedican a poner en marcha y a ejecutar

dijeron que había que hacer un recálculo que incluso se llegó a llevar al consejo vasco de finanzas ustedes saben que además eso tenía bastante más apoyo

por parte de las diputaciones forales o de algunas de ellas en aquel consejo vasco de finanzas ustedes tienen la mayoría absoluta

amagaron con usarla para poner ese recálculo en marcha y para que esos tres impuestos pudieran formar parte de los recursos además hablaron de trescientos millónes

para los presupuestos vascos de cien millónes para las instituciones locales y forales es decir que lo tenían cuantificado todo esto a fecha de hoy

gravísimo en la situación económica que vive euskadi en la situación presupuestaria que vive euskadi en la limitación en la superlimitación de recursos

hacer choque a la crisis económica es gravísimo que usted esté sin reacción ante un asunto de tanta importancia ante un recurso tan importante sabiendo que además no solamente este es uno de los recursos

y usted lo sabe hay unos presupuestos que nacen con una insuficiencia presupuestaria extraordinaria hoy mismo está haciendo declaraciones miembros de su gobierno

se puede tocar nosotros le hemos invitado le hemos propuesto hace mucho tiempo a que tuviéramos una posición política más firme y más fuerte en relación al gobierno de españa para

porque además no se lo merece euskadi y porque además el comportamiento que ha tenido euskadi en ese aspecto en relación con otras comunidades autónomas y con el propio gobierno de españa

de déficit es sobradamente edificante como para poder

por un déficit distinto ustedes saben que hay otros recursos de otro tipo

que también pueden suponer participación en los recursos de los presupuestos vascos para poder proceder después a los gastos

márgenes que hay otros márgenes y nosotros se lo estamos pidiendo los socialistas vascos le estamos pidiendo que trabaje en otros márgenes porque es gravísimo que no se haga en esta situación económica y social en la que vive euskadi y bueno parece

no quiere reaccionar mire el viernes pasado aquí usted dijo está en el acta

si podemos contar con nuevos ingresos a lo largo del año y es como consecuencia de una modificación fiscal

podemos contar con nuevos ingresos desde el uno de enero de dos mil trece podemos contar con la previsión de esos nuevos ingresos desde el uno de enero de dos mil trece y a eso es a lo que

apelando a que reaccione y a que tenga en cuenta esto porque si es cierto como dice usted

la pregunta es por qué y para qué los esconde por qué no están reflejados en este proyecto de presupuesto no sé cuál es la razón me gustaría porque

usted se resiste se niega a incorporar a los presupuestos unos ingresos que sabe que están cuantificados por las propias diputaciones y que

han sido decepcionados desde el punto de vista político por el señor erkoreka que ha hecho manifestaciones al respecto

que también ha hecho manifestaciones al respecto y que en un momento determinado estuvieron muy ilusionados con esa posibilidad de incorporar esos recursos al presupuesto pero de repente toda esa ilusión se ha convertido en una risa fácil ahora pero los trescientos millónes dónde están

y me parece que esto es bastante dramático en la situación económica que vive el país como para que

un juego de palabras sin más estamos ante una responsabilidad que tienen que gobernar una responsabilidad de llevar hasta el último céntimo que se pueda obtener en las diputaciones forales a través de la fiscalidad de los ciudadanos de llevarlo al presupuesto

porque la educación lo necesita porque la inversión pública lo necesita mire hoy mismo ayer salía una

políticas anteriores en el gobierno secretaria general de confebask diciendo que los presupuestos no sirven para enfrentarse a la crisis económica no sirven para la reactivación económica no sirven para el empleo

y es bastante difícil que puedan servir para este tipo de cosas en la parte correspondiente que le toque a lo público si carecen de los recursos suficientes

y que por un lado oculta que el gasto social también ha sido recortado pero incluso ha dado a entender que le gustaría más gasto social pero bueno eso es otra parte y eso

pero confebask le dice que los presupuestos que están haciendo

la reactivación económica y eso a dos días de que ustedes hayan presentado un plan de empleo luego de qué plan de empleo estamos hablando qué es lo que le falta a estos presupuestos fundamentalmente le falta a estos presupuestos recursos

que usted los está viendo y que se empecina en no llevarlos adelante por lo tanto

de reaccionar se la dimos en aquella interpelación se la hemos dado ahora se la estamos dando todos los días se la estamos dando permanentemente nosotros queremos que haya más recursos los recursos entran a través de los ciudadanos en las haciendas forales no son recursos del gobierno no son recursos de las diputaciones son recursos de los ciudadanos que hay que devolverlos a los ciudadanos que mediante la acción política

desde el gobierno y que resuelva este parlamento hay que devolvérselo a los ciudadanos

hay una parte que se retiene no se está haciendo esa política de devolución a los ciudadanos yo creo que ustedes tienen demasiada ambición de poder demasiada ambición de estar en el gobierno pero muy poca ambición de ciudadanía muy poca ambición de llevarles a la ciudadanía lo mejor

pública en los problemas que tiene la sociedad y a mí me parece que esto es lo que realmente debiera de preocuparles ustedes han tomado una decisión profundamente equivocada el consejo vasco de finanzas usted sabe que

y que contó con la colaboración de ustedes que tienen la mayoría absoluta es una decisión fallida es una decisión falsa es una decisión fraudulenta cuando se tiene la plena conciencia en el consejo vasco de finanzas

y lo hacen los representantes del gobierno vasco de que hay más recursos y no se ponen eso es falsear la realidad

probablemente porque el consejo vasco de finanzas se puede permitir el lujo de actuar sin las suficientes reglas y los suficientes controles para decir

es gravísimo que lo público sabiendo constatando afirmando documentando que tiene más recursos no lo ponga a disposición de los ciudadanos

ni estamos ante algo que se pueda abordar o tratar frívolamente

muy grave que es que un gobierno coja todos los recursos de sus ciudadanos y lo ponga en disposición de esos ciudadanos y ustedes que han constatado que tienen más recursos que tienen más capacidad han optado por la vía de los recortes

nos dice de dónde quieren quitar ustedes para decir de dónde tienen que poner

los socialistas en todas y sabe de dónde queremos quitar de lo que ocultan ustedes de esos impuestos de la falta de agresividad que tienen ustedes

de ahí queremos quitar queremos quitar de una negociación en relación al cubo para obtener también recursos que también de ahí se pueden sacar y que ustedes dicen que se pueden sacar es decir

económicas que se pueden incorporar a los presupuestos que se pueden dotar a los presupuestos de ahí queremos sacar nosotros los recursos para poner en qué partidas en todas

ustedes hacen una política expansiva en recortes y a continuación digan no y ahora jueguen con esta política de gastos

si es que esa política de gastos está condicionada por esa política de ingresos y esa política de ingresos está trucada es una política

y por lo tanto asuman la responsabilidad de estar al frente de un gobierno asuman la responsabilidad

por toda la ciudadanía y devuelvan a la ciudadanía lo que es de la ciudadanía y de la ciudadanía son esos recursos

para eso hemos presentado esta moción para que salgan a flote y para que se incorporen a los presupuestos y si usted no lo hace usted sabrá que tiene este déficit esta tara

y que seguramente condicionará muchas de las posibilidades políticas que usted tendrá también para hacer como gobierno pero bueno como le he dicho en algún momento si

las cosas concretas no le interesan si está de verdad interesado por gobernar

esos impuestos y otras partidas presupuestarias al capítulo de ingresos porque euskadi lo necesita porque la ciudadanía vasca lo necesita y porque no es de recibo que usted se lo niegue

ni tara ni ningún problema de los que usted hace referencia ni ansiedad por estar en el gobierno ustedes tendrán que revisar qué les llevó a ustedes en su momento a tomar determinadas decisiones a continuar en el dos mil doce poniendo

a no aprobar directrices económicas en junio del dos mil doce para poder hacer en tiempo y forma en una situación especialmente critica económicamente como en la estamos viviendo

dicen dos diputaciones dijeron que no podían aportar plena confianza dice usted pero dos de las diputaciones dijeron que no podían que no estaban en situación de aportar realmente esa revisión de la previsión de ingresos creo que hay que tener

criterios técnicos para decirlo por lo tanto aunque una de ellas la de bizkaia sí

se mostró a favor de hacerlo dos de ellas no y nosotros y el gobierno respeta lo que desde otras instituciones públicas

es un engaño cómo puede usted decir eso ustedes en el presupuesto del dos mil diez después del consejo vasco de finanzas de octubre

de ingresos e incorporaron un crédito

de doscientos cuarenta y nueve millónes de euros además se cuenta con una cantidad extraordinaria de inversión de doscientos cuarenta y nueve millónes de euros que ha salido por unos mayores ingresos y así se ha establecido en el consejo vasco de finanzas y por lo tanto

con la posibilidad de ejecutar un plan de doscientos cuarenta y nueve millónes de euros parte de los cuales irán destinados a la inversión en proyectos estratégicos que también son proyectos municipales que también son proyectos de corporaciones locales y también irán a proyectos de innovación en los cuales también participan

si fue posible entonces si estuvo bien hecho entonces

las afirmaciones que usted ha hecho hay tres impuestos dice usted efectivamente y usted en su moción hace referencia a tres le voy a decir la actualización de balances a la que se refiere usted en el consejo vasco de finanzas que se celebró el veintitrés de octubre de dos mil doce no estaba vigente

los textos normativos se aprobaron en diciembre en madrid la ley de acompañamiento a los presupuestos de dos mil trece el dieciocho de diciembre

el veintiocho de diciembre en la diputación de álava y posteriormente el cinco de febrero foral de gipuzkoa por tanto cuando se establecieron esos ingresos por las diputaciones de bizkaia pnv gipuzkoa bildu pp en álava

esa previsión ha sido en el intervalo de tiempo que va de octubre de dos mil doce a febrero de dos mil trece cuando se aprueba toda esta normativa

hacer una revisión de las previsiones el gobierno entiende que puede ser y dos diputaciones dicen miren nosotros no lo podemos hacer y por tanto

acuerdo interinstitucional que es el mandato que el gobierno tiene recibido del lehendakari en su debate de investidura en esta cámara se decide sacar del orden del día hace referencia usted también al impuesto del juego es curioso que lo diga porque sabe cuándo se aprobó

en mayo del dos mil once estando ustedes gobernando aquí

cómo hacemos la estimación porque no sabemos cuál es el punto de conexión ni sabemos nada la verdad es que hay que tener un poco de prudencia cuando uno está diciendo las cosas

habla del límite del déficit pelear por el límite del déficit dice sabe usted quién cambió la constitución en quince días para constitucionalizar el cumplimiento del límite del déficit público en quince días la constitución la cambiaron para que fuera obligatorio cumplir con ese límite

ustedes habla de otros recursos y usted habla del cupo hablan del cupo

sin resolver las discrepancias entre las instituciones de la comunidad autónoma de euskadi y en el estado y en el cálculo

no creo que sea necesario pero ustedes han gobernado del dos mil nueve al dos mil doce los socialistas han gobernado del dos mil nueve al dos mil doce estas discrepancias en la interpretación del cupo se inician en la liquidación que se hace cuando transcurre

a treinta y uno de diciembre de dos mil once los descuentos que el estado ha realizado ascienden a trescientos sesenta y seis coma ocho millónes de euros cuyo detalle es el siguiente ley orgánica de educación educación infantil o

setenta y uno coma cuatro millónes de euros la ley de dependencia la aportación extraordinaria de dos mil nueve por asignación de una cuantía menor al seis coma veinticuatro por ciento de los créditos destinados a la financiación

garantizada la discrepancia asciende a veinticinco coma tres millónes de euros en dos mil nueve cuando estaban ustedes índice de actualización por ciento ochenta y tres coma cinco millónes de euros en dos mil once cuando gobernaban ustedes tanto aquí como allí políticas activas de empleo por exclusión de partidas previstas en el real decreto de traspaso mil cuatrocientos cuarenta y uno de dos mil diez e inadecuación de las certificaciones

por ochenta coma cinco millónes de euros en dos mil once cuando gobernaban los socialistas cuando gobernaban ustedes aquí y allí y otros seis millónes en distintos conceptos ustedes quieren que incluyamos ahora este importe en los ingresos cuando han gobernado todo este tiempo e incluso con presidentes socialista en madrid como le digo y no han sido capaces de resolver las discrepancias ojalá lo hubieran resuelto

ustedes que han dejado sin renovar la ley quinquenal del cupo que vencía en noviembre de dos mil once con gobierno socialista en madrid

exigen que incrementemos los ingresos cuando como le he dicho en mayo del dos mil once entra en vigor el impuesto sobre actividades del juego y no lo concertaron a pesar de que los socialistas gobernaban en madrid menos aún después con rajoy claro ustedes que salieron corriendo a la prensa hablando de trucos contables que se considera bochornoso

la propuesta de recalculo de ingresos propuesta por bilbao todo esto es lo que ustedes han hecho o han dejado de hacer y lo que han dicho todo esto no da señor prieto lugar a interpretación los deberes sin hacer y además seis mil quinientos millónes de deuda

de deuda los socialistas en realidad

lo que están buscando son excusas para votar en contra del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno hasta el martes doce de marzo

presenta el proyecto de presupuesto la línea roja socialista

en el gasto pero hete aquí que el proyecto de presupuesto tiene sorpresa porque a pesar de tener una reducción de diez coma ocho por ciento por lo que habíamos recibido pues resulta que

que es más del setenta por ciento del presupuesto de salud pues no tiene prácticamente reducción un uno

o cuando ven que prestaciones sociales como la renta de garantía de ingresos la pensión complementaria de vivienda las ayudas de emergencia social

están intactas intactas a pesar de la reducción del presupuesto insisto si los socialistas hubieran defendido la flexibilidad en el establecimiento del déficit en lugar de constitucionalizarlo

del cupo si hubieran renovado en tiempo y forma la ley quinquenal del cupo si hubieran concertado los nuevos tributos si no se hubieran echado las manos a la cabeza el gobierno propuso la revisión de ingresos los ingresos tal vez solo tal vez serían mayores pero no lo hicieron y ahora que el gobierno tiene que gestionar lo que ha recibido ahora tiene que gestionar lo que ha recibido y lo tiene que gestionar señor prieto con responsabilidad con seriedad con discreción y con prudencia